señoras y señores siguiendo con los criterios que ha planteado nuestro grupo a la mañana en el debate general sobre este

nosotros vamos a presentar una serie de resoluciones basadas en cuatro principios cuatro premisas que han sido también explicadas esta mañana

para el mantenimiento de los servicios públicos en segundo lugar para intensificar la lucha contra el fraude fiscal en tercer lugar para defender un reparto justo de la carga tributaria

y en cuarto lugar para plantear modificaciones tributarias que eviten la elusión fiscal en este sentido hemos presentado

resoluciones que voy a tratar de explicarlas presentarlas y extractarlas en el tiempo

la primera resolución se refiere a los recursos públicos para el bienestar donde lo que queremos es que el parlamento manifieste su compromiso inequívoco con el estado de bienestar con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales con los mecanismos de protección social y con el impulso de la actividad económica generadora de empleo

la suficiencia de ingresos la propuesta número dos que se refiere a la armonización fiscal en el parlamento lo que queremos es que el parlamento vasco considere que euskadi necesita un sistema tributario armonizado con una presión fiscal global equivalente para todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma vasca y que responde a criterios de progresividad justicia equidad tanto en la recaudación como en la distribución de los recursos

y acuerde la política fiscal para la comunidad autónoma vasca en la resolución número tres

trabajen conjuntamente en un compromiso colectivo para hacer frente a las necesidades de sostenimiento y garantía

para fomentar la corresponsabilidad fiscal de la ciudadanía para luchar contra el fraude para defender un reparto justo de la carga tributaria y para realizar modificaciones normativas para que se evite la elusión fiscal la

en la lucha contra el fraude y en este sentido se propone un programa de colaboración interinstitucional en la lucha contra el fraude que permita presentar periódicamente los medios y las medidas

este aspecto se insiste también en que para lograrlo es imprescindible

de lucha contra el fraude fiscal en la propuesta número cinco sobre la inspección tributaria

de un plan conjunto de inspección que emita un informe anual de gestión e inspección tributaria

se trata de que las diputaciones en colaboración con el gobierno de navarra el de españa la agencia tributaria y la seguridad social establezcan la interconexión informática en tiempo real para combatir el fraude la propuesta número siete habla de un plan frente a bolsas de fraude y el objetivo es fijar un plan de prevención y de atención de esas bolsas de fraude la propuesta número ocho

y lo que se quiere es que el conjunto de las instituciones municipales forales autonómicas estatal amplíen la cesión de datos y promuevan

individuales para anular vías que permitan el fraude la resolución nueve habla sobre el historial del contribuyente y en ella se propone

y un registro de obligados tributarios de especial riesgo en la propuesta diez se habla del coste de los servicios públicos y para que

a los usuarios de los servicios con el propósito de informar exclusivamente de su coste en la

se habla de aumentar las sanciones a defraudadores y se plantea que el objetivo es que se aplique una normativa disuasoria exigiendo el pago completo de la cantidad defraudada y los intereses de demora y aumentando las sanciones tributarias al doble de lo que debieran haber pagado si hubieran declarado correctamente y además se plantea que las personas

que hayan sido sancionadas fiscalmente pierdan los beneficios fiscales becas subvenciones y además que las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas fiscalmente no puedan contratar con la administración pública vasca durante un período mínimo de tres años

y lo que queremos es que se realicen campañas que promuevan la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la denuncia social ante el fraude y que se publiquen los nombres y sanciones impuestos a los defraudadores

la resolución trece habla de tributar según renta

para reducir el pago de impuestos socava los principios de equidad y progresividad y por eso planteamos que haya una revisión de la consideración

que haya una revisión en el tratamiento de las rentas irregulares que haya una reconsideración en el tratamiento de las retribuciones

que haya una revisión en los beneficios fiscales en caso de rescate quinquenal y que se suprima la modalidad de estimación

que habla sobre el impuesto de patrimonio lo que queremos es que el parlamento vasco apoye la armonización del impuesto del patrimonio en los tres territorios que

que ya ha sido aprobado en territorio de gipuzkoa en la propuesta número quince

y ahí lo que queremos es que se regule la tributación de las ganancias desde el fallecimiento del causante hasta el ejercicio del poder testatorio en la resolución dieciséis sucesiones y donaciones

sobre sucesiones y donaciones que las donaciones pasarán a tributar en su integridad mientras que para el caso de las sucesiones se

a los familiares directos que antes estaban exentos pasen a tributar

la resolución diecisiete habla del aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y ahí se trata de aumentar el tipo general del impuesto de transmisiones

se tributará al uno por ciento las anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos la propuesta dieciocho que habla de deducciones por vivienda

un tipo reducido en función de la renta del contribuyente y de los metros cuadrados de la vivienda en la propuesta diecinueve se habla de la deflactación de la tarifa del irpf y se trata de hacer que la deflactación anual de la tarifa del irpf y la revisión de las deducciones para que se aplique en el mismo porcentaje de variación que experimente el ipc en la propuesta número veinte

y se trata de corregir los tramos de la tarifa general en el impuesto sobre la renta de las personas físicas introduciendo nuevos tramos como serían las bases liquidables de más de ciento setenta y siete mil seiscientos cincuenta euros tributando al cuarenta y nueve por ciento las bases de ciento veintiuno mil ochocientos veinte

al cuarenta y seis por ciento en la propuesta número veintiuno

que tiene que ver con el rechazo también a la reforma laboral y en coherencia con ese rechazo a esa reforma aprobada por el gobierno de españa se propone un tratamiento específico

las que por acuerdo entre los trabajadores despedidos y las empresas superen los veinte días por año trabajado en el caso de que el cese de la relación sea por razones objetivas el tope de exención será de sesenta mil euros y en los casos que se reconozca la improcedencia del despido

las cantidades correspondientes a cuarenta y cinco días por año trabajado sea cual sea la cuantía resultante

del dinero que las diputaciones forales pagan al cupo para que las reformas laborales las paguen los que los hacen en la propuesta número veintidós se habla del aumento de la tributación de las rentas de capital y aquí lo que se propone es que el tipo impositivo para las rentas del ahorro tengan una tributación del veintiuno por ciento

a treinta mil euros y del veinticinco por ciento en las rentas a partir de treinta mil uno euros anualmente seguirá equiparando el tipo aplicado de renta de capital

los tipos de las rentas de trabajo en un periodo de ocho años la resolución veintitrés

para las nuevas adquisiciones no para las que ya están establecidas y se propone

de vivienda y para las nuevas adquisiciones se mantendrá el dieciocho por ciento de deducción para bases imponibles inferiores

en la propuesta veinticuatro se habla de deducciones por rehabilitación y lo que

la deducción general del dieciocho por ciento por gastos de rehabilitación en la propuesta veinticinco sobre límites a desgravaciones por aportaciones a sistemas de previsión social lo que queremos es limitar las desgravaciones por aportaciones a los sistemas

y queremos que la normativa autonómica sobre previsión social se revise y se determinen los porcentajes adecuados para garantizar tanto la finalidad de estas medidas de previsión social como la suficiencia de los ingresos fiscales en la propuesta veintiséis sobre bonificaciones y deducciones queremos que las bonificaciones y deducciones se apliquen en función de la capacidad de renta del contribuyente en la resolución veintisiete modificación deducciones por edad

teniendo en consideración la capacidad de renta del contribuyente y eliminando por ello las deducciones a las rentas

euros en la propuesta veintiocho sobre el impuesto de sociedades

es revisar el impuesto de sociedades por ser un impuesto que se aplica a los beneficios empresariales garantizando un porcentaje mínimo de ingreso fiscal equiparado al tipo mínimo de las rentas de trabajo o rentas de capital y revisando las deducciones que se aplican cada tres años para comprobar que están cumpliendo

la resolución veintinueve de ayuda a las pequeñas y medianas empresas lo que se propone es que el tipo impositivo aplicable baje del veinticuatro al veintitrés por ciento en la propuesta de ayudas al empleo lo que proponemos es que el impuesto de sociedades incluya un tipo especial reducido

trece catorce y quince para las empresas de menos de veinticinco trabajadores que hayan mantenido y mantengan el empleo y respeten los convenios colectivos del sector la propuesta treinta y uno de bonificaciones para inversiones de interés social lo que queremos es que se elimine

a la reinversión de bienes de equipo o instalaciones para la mejora de la competitividad o al mantenimiento y creación de empleo de calidad la propuesta treinta y dos

en el impuesto de sociedades sobre los beneficios netos que se destinen al reparto de dividendos

que puedan rebajar el tipo general para aquella empresas que apuesten por la diversificación

la capitalización para efectuar futuras inversiones etcétera en la propuesta treinta y cuatro ayudas al emprendimiento

a las iniciativas de emprendimiento se les favorezcan y que se consideren exentas de tributación las plusvalías obtenidas en las trasmisiones de acciones o participaciones de entidades de nueva creación

y en un tiempo de permanencia superior a tres años o inferior a diez

la eliminación de todas aquellas figuras tributarias que permiten la instrusión fiscal y en este sentido a eliminar la figura de las sociedades de promoción de empresas que está actualmente en vigor en la propuesta número treinta y seis

de cuota mínima a empresas inactivas en la propuesta treinta y siete queremos penalizar la reducción de plantillas y para eso proponemos un incremento de tres puntos porcentuales sobre el tipo general del treinta por ciento para las empresas con beneficios

en la propuesta número treinta y ocho de revisión fiscal del régimen de cooperativas proponemos la revisión de la consideración fiscal del régimen de cooperativas bajo la perspectiva de volumen de negocio mantenimiento del empleo y revisión

fiscal sobre beneficios en la treinta y nueve sobre fiscalidad a favor del empleo

de las deducciones citadas y que la cantidad resultante sea destinada políticas de gasto ligadas a la creación de empleo

queremos incentivar todas las modalidades impositivas las apuestas que los ciudadanos y las empresas hacen por reducir comportamientos agresivos al medio ambiente y también por invertir

en la cuarenta y uno la reforma del sistema financiero internacional lo que queremos

de ese sistema financiero internacional y en concreto de las transacciones financieras con el objetivo de incrementar la estabilidad financiera

y de obtener recursos para financiar bienes públicos globales

un tributo a las transferencias internacionales ya que con los ingresos derivados de la misma

la ayuda al desarrollo y que euskadi participe en ese impuesto de acuerdo con el concierto económico la resolución cuarenta y dos

el ibi y lo que proponemos es que se hagan las modificaciones

y las normas que sean necesarias para evitar injustificables exenciones del ibi y de otros impuestos a confesiones religiosas

religiosas en euskadi y transitoriamente se compensará a través del cupo esta pérdida de capacidad económica de los ayuntamientos en la propuesta cuarenta y tres actualización del catastro proponemos que se actualice el catastro

con posterioridad al año dos mil uno la resolución número cuarenta y cuatro que es un informe sobre presión fiscal lo que proponemos es que anualmente eudel y las diputaciones forales elaboren un informe sobre la presión fiscal de las entidades locales

de aportaciones hay una resolución número cuarenta y cinco que habla del impuesto de actividades económicas y que se plantea que

de dos millónes de euros a uno millón de euros en el impuesto sobre dichas actividades

la resolución cuarenta y seis se refiere al impuesto sobre depósitos bancarios y lo que se propone es la aprobación del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito que contabilicen los depósitos en las sucursales ubicadas en los territorios históricos

de ciento cincuenta millónes de euros de cero coma cuatro por ciento hasta seiscientos millónes

de los seiscientos millónes la resolución número cuarenta y siete

y lo que queremos es modificar el periodo de tiempo en el que el impuesto de transmisiones está exento para las viviendas que adquieren las entidades financieras rebajándolas

en la resolución número cuarenta y ocho a favor del derecho a la salud y contra el copago sanitario lo que planteamos es que con el fin de que la ciudadanía vasca no vea mermado su derecho a la salud

por las facturas farmacéuticas que será abonado por el gobierno vasco a través de las aportaciones en el caso de las personas que por su bajo nivel de ingresos no tengan que hacer la declaración de renta o no tengan derecho a devolución se

para que no recaiga sobre ellos el aumento del pago farmacéutico la resolución número cuarenta y nueve impacto tributario de las leyes lo que se propone es que con los proyectos de ley

se acompañe obligatoriamente un informe sobre consecuencias tributarias

la ley la propuesta de resolución número cincuenta sobre desencuentros en el órgano de coordinación tributaria

en los casos que existiese en el seno del órgano de coordinación tributaria desencuentros importantes y para ello tras los trámites pertinentes

una declaración sobre las cuestiones que pudieran ser discrepantes hay una propuesta número cincuenta y uno que habla del foro permanente de fiscalidad

en esta cámara para que cuando se den circunstancias que motiven una modificación fiscal en cualquiera de los tres territorios se dé conocimiento a los representantes del conjunto de los vascos la propuesta número cincuenta y dos digamos que es un cierre que tiene que ver con su inicio

y lo que se propone es seguir trabajando en el objetivo de alcanzar una reforma fiscal que garantice la suficiencia de los recursos públicos para llevar a cabo

para salir de la crisis y mantener los derechos sociales y el estado de bienestar bien como han visto fieles a nuestro discurso de esta mañana fieles a nuestro objetivo político de hablar de fiscalidad

de las palabras a los hechos y de acuerdo con esos cuatro principios que he defendido en el inicio

los socialistas nos hemos tomado la preocupación el trabajo el esfuerzo que queremos compartir con todos ustedes de traer cincuenta y dos resoluciones y de ver cómo ustedes

intervención muy clarificadora en relación a la postura del partido popular coherente

que han tenido nuestro portavoz en materia económica la mañana hoy paso yo también a

y explicar las propuestas de resolución que ha presentado

en este pleno como decía la mayoría de las propuestas presentadas sí que hemos introducido alguna novedad son las propuestas que se aprobaron en el anterior pleno monográfico que tuvimos antes de acabar la anterior legislatura y que fueron aprobadas en este pleno por lo tanto señorías no habrá mucho inconveniente en que vuelvan a ser aprobadas

no caigan en contradicciones planteamos veinte propuestas de resolución absolutamente realistas coherentes y efectivas

primordial y prioritario de la recuperación económica de incrementar la actividad empresarial de nuestras empresas de nuestro tejido productivo

incrementar el empleo que aumente el número de cotizantes que aumente la recaudación y por lo tanto que aumenten los ingresos ese es el objetivo del partido popular y ese es el objetivo desde luego que nos marcamos y por el que estamos trabajando en las diferentes administraciones

es una herramienta fundamental para promover la recuperación económica

el futuro del estado de bienestar y de los servicios públicos esenciales

a que el gobierno vasco y las diputaciones forales lleguen en el seno del órgano de coordinación tributaria a acuerdos en materia tributaria que se hagan las pertinentes modificaciones en la legislación tributaria pero siempre respetando el modelo de distribución copendencial establecido en la constitución española

el concierto económico y la ley de territorios históricos todo

las instituciones de los territorios históricos que son las competentes tributaria también hacemos referencia en nuestras propuestas de resolución a respetar y salvaguardar como no podía ser de otra forma los principios de solidaridad equidad progresividad estabilidad seguridad jurídica que son elementos constitutivos esenciales de cualquier sistema tributario con el fin también de que nuestro sistema tributario siga siendo moderno

en definitiva señorías medidas fiscales que se dirijan a favorecer las rentas más bajas a favorecer la actividad empresarial

y la innovación en nuestras empresas la generación de empleo la competitividad de las empresas vascas los pequeños ahorradores autónomos pequeñas

la actividad económica porque sin duda uno de los problemas como también ha explicado de forma muy clara nuestro portavoz esta mañana económico antón damborenea el principal problema que tenemos es el desempleo

y una de las causas directas del desempleo en todos los sitios

es la disminución de la actividad económica por lo tanto hay una necesidad obvia imperiosa de reactivar la economía vasca

poner la política fiscal al servicio de la reactivación de la economía vasca de la competitividad de nuestras empresas del crecimiento económico en definitiva de la recuperación económica impulsar políticas también

y en ese sentido hacemos una propuesta de resolución específica en relación a esta cuestión el eje central digo de nuestras propuestas es fomentar la competitividad en nuestro tejido productivo y por eso proponemos

estableciendo incentivos para ello proponemos también que se bonifiquen el tipo a quienes reinviertan los beneficios en fondos propios de las empresas

el empleo para nosotros estos tres aspectos son cruciales para la recuperación económica para fomentar la competitividad de nuestro tejido productivo y ayudar

emprendedores que son en definitiva el motor de nuestra economía

sí proponemos incrementar las deducciones a las familias con

con el fin de aliviar la carga tributaria a las familias tenemos

más bajas no solo de españa sino de europa

en este sentido y también con el objetivo como he dicho de aliviar la carga tributaria a las familias la lucha contra el fraude también ocupa

de resolución consideramos imprescindible implicar al conjunto de los ciudadanos a la lucha contra el fraude esto es una cuestión de toda la sociedad

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias situar al fraude con un comportamiento

promover la firma de convenios con colectivos de profesionales y empresarios individuales para anular vías o resquicios que permitan el fraude

para luchar contra el fraude de aquellos contribuyentes que operen en más de un territorio la suscripción de convenios con otras entidades para la consecución de datos

intensificar también la colaboración para cuando se detecten entre las diferentes instituciones para cuando se detecten datos sobre fraude laboral fraude en las ayudas sociales

para investigar posibles situaciones de fraude fiscal

y para seguir defendiendo el aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales en definitiva señorías

a combatir el fraude fiscal que como decía es una cuestión que nos compete a todos y también

incentivar nuestra economía nuestro tejido productivo con propuestas muy concretas

que son las que he comentado y vuelvo a reiterar hemos defendido y hemos traído aquí propuestas de resolución que ya han sido aprobadas

obstáculos para que salgan aprobadas sí tengo que decir

grupos que han tenido una posición favorable a la negociación con este grupo con el partido popular

de llegar a acuerdos y tengo que decir que obviamente que aquellos grupos que no han querido negociar con el partido popular pues no hemos tenido oportunidad de hacerlo y por lo tanto no hemos podido negociar en relación
propuestas y actuaremos obviamente como no puede ser de otra forma en consecuencia nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea jarraian eh bildu taldearen

sí gracias presidenta buenas tardes a todos en nuestro caso hemos presentado cuarenta propuestas de resolución que tratan de concretar de la mejor manera posible los argumentos planteados

de la mañana efectivamente algunas propuestas de resolución son más concretas que otras otras son más bien genéricas y otras quizás sean incluso hasta filosóficas en todo caso creo que muchas de ellas pueden ser compartidas por la mayoría de los grupos de esta cámara

no sean aprobadas en todo caso hemos tratado de plasmar en estas cuarenta propuestas de resolución

y en concreto los argumentos planteados también hoy por la mañana

son propuestas de resolución que plantean la reforma del modelo institucional son propuestas de resolución que plantean la reforma del modelo foral impulsando para ello las modificaciones legales que sean necesarias ley de territorios históricos

constitución española proponemos también muy directamente que las competencias fiscales hoy en manos de las juntas generales de los territorios históricos

a este parlamento lo proponemos claramente en una de las propuestas de resolución

un buen abanico de propuestas de resolución relacionadas con la lucha

estas propuestas de lucha contra el fraude fiscal digamos que las hemos preferido dividir sabemos que en este parlamento hay algunos grupos que están a favor de impulsar planes conjuntos de lucha contra el fraude fiscal otros no en todo caso hemos querido dividirlas porque

dentro de lo que sería la elaboración de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal digo que por esa razón

hemos preferido separarlas también proponemos que este parlamento vasco diga que se opone radicalmente a cualquier medida de amnistía fiscal y en concreto a la última impulsada por el gobierno

proponemos también instar a las juntas generales o a las diputaciones forales a aplicar estrictamente su normativa foral del irpf en lo que se refiere al tratamiento de los rendimientos de trabajo generados en un periodo superior a dos años y no se obtengan de forma

interpretaciones ventajosas de dicha normativa para determinados grupos profesionales proponemos también revisar la actual tributación de las rentas de capital para que se tienda la equiparación

tratamiento de las rentas del trabajo y por lo tanto la eliminación de los sistemas duales creo que algún

una propuesta de resolución en esos términos planteamos también eliminar o corregir las deducciones actualmente lineales

proponemos analizar y limitar la deducción por gastos personales en el impuesto de sociedades proponemos plantear también

en las deducciones por adquisición y alquiler de vivienda hay una muy concreta en concreto proponemos pedir al gobierno de españa que remita a la fiscalía la información que tenga sobre capitales de posible origen ilícito

con la llamada amnistía fiscal así como a garantizar el acceso de los inspectores de la agencia tributaria a toda la documentación es decir que colabore

al ministerio fiscal de acuerdo con lo dispuesto en la ley general tributaria digamos que es una propuesta novedosa y de mucha actualidad proponemos también defender que la fiscalidad de las empresas no obstaculice el crecimiento económico ni reduzca la capacidad competitiva de las empresas pretendemos que este parlamento también exprese su rechazo a que la regulación tributaria pueda ser utilizada por sociedades y personas jurídicas para la elusión de sus obligaciones fiscales proponemos también que se analice la eficacia de deducciones y regímenes especiales del impuesto sobre sociedades

con la iglesia católica y las restantes confesiones religiosas en alguna ocasión hemos debatido también este asunto digamos que nuestra propuesta es

a las cortes generales a acometer la oportuna reforma del acuerdo de tres de enero de mil novecientos setenta y nueve con la santa sede sobre asuntos económicos

religiosa a fin de establecer los mecanismos y criterios necesarios para distinguir entre aquellas actividades de la iglesia católica y las restantes confesiones religiosas

a la promoción de la fe religiosa aquellas otras funciones o actividades de índole social o asistencial y finalmente los rendimientos de aquellos bienes o actividades afectos a cualesquiera explotación de índole económico por un lado las actividades de índole social o asistencial tengan los mismos beneficios fiscales que los que disfruta cualquier entidad sin fin o animo de lucro y que las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe dogmas o cultura religiosa

afectas a una explotación económica carezcan de beneficios especiales teniendo a efectos impositivos

en las mismas condiciones proponemos también instar al gobierno vasco y a las diputaciones forales a aclarar las consecuencias de las vacaciones fiscales

que se impongan proponemos defender la necesaria armonización en el conjunto del país vasco del denominado impuesto sobre el patrimonio o renta

aquí tengo que hacer un inciso cuando hablamos de armonizar atiendan ustedes porque esto es importante

del denominado impuesto sobre el patrimonio o renta de las grandes fortunas

al impuesto aprobado en gipuzkoa con el que no estamos de acuerdo estamos hablando de la posible creación de un impuesto sobre el patrimonio

pero la necesidad de que este impuesto esté armonizado

ahora continuo para pedir también la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones cedido a las comunidad autónomas para evitar tratos discriminatorios y fenómenos de deslocalización estableciendo un gravamen y un mínimo exento comunes a todas

porque creo que ha sido recientemente aprobado al menos el gobierno de españa así lo ha defendido la introducción de un impuesto sobre las operaciones financieras conocido como

y finalmente proponemos que este parlamento diga que defiende el impulso a una política fiscal común europea que complemente la moneda

por otro lado hemos llegado a dos enmiendas de transacción con el partido nacionalista vasco que por otro lado también debo decir no creo que ningún otro partido político se oponga porque son de sentido común

en conclusión propuestas de resolución que lo que tratan es de habilitar

fiscal mas justo progresivo e igualitario posible algunas propuestas de resolución digamos que las planteamos para pretender cambiar

se adaptan más a este modelo que tenemos porque efectivamente en el corto plazo no podemos cambiarlo y esperamos que

respecto al resto de propuestas de resolución presentadas por los grupos

únicamente debo decir que algunas podemos compartirlas

y como dijo hace un año el señor arieta pues votaremos a favor de aquellas con las que estemos de acuerdo votaremos en contra de aquellas que no compartamos

arratsalde on guztioi antes de presentar las propuestas de resolución que hemos registrado para el debate de hoy creemos necesario hacer un par de consideraciones la primera que corresponde a las instituciones competentes llevar adelante las iniciativas

mayoritariamente los órganos forales y bajo el que deberían llevarlo

tener el mayor consenso posible eaj pnv nunca hemos rehusado el debate en torno a la fiscalidad del ámbito tributario siempre hemos

ya sean los órganos forales en este parlamento consensuando

también haciéndolo con el partido socialista hoy tampoco rehusamos el debate no lo hemos rehusado y hemos presentado unas propuestas de resolución en las que el pnv trabaja para que en el ámbito que corresponda

casi todos compartimos que debe cumplir el sistema tributario todos defendemos la progresividad la equidad la redistribución de la riqueza

en sólidos pilares que garanticen un óptimo

y gastos públicos y además facilitar un escenario que propicie la reactivación económica y la generación de riqueza así como la recuperación del empleo

creemos que las propuestas de resolución que presentamos hoy han de marcarse dentro de esa política general que es donde las distintas políticas fiscales y tributarias

nuestras propuestas de resolución que hemos presentado en el primer bloque porque hemos presentado dos en tres bloques este primer bloque lo hemos dividido en tres